como saben ustedes paco larrañaga es un joven de origen vasco y filipino que fue juzgado y condenado en mil novecientos noventa y nueve el cinco de mayo a prisión y fue condenado además a reclusión

el cuatro de febrero de dos mil cuatro por un cambio legislativo en filipinas fue condenado a muerte y después se le dicha pena por cadena perpetua en el año dos mil seis gracias a

a españa a cumplir condena donde actualmente cumple condena en martutene

la cadena perpetua la audiencia nacional tradujo esa pena de filipinas en una de cuarenta años de reclusión en el año dos mil diez la

el indulto a las autoridades filipinas el gobierno español trasladó a las autoridades filipinas el apoyo a dicha solicitud

acordado y firmado una transaccional con el grupo popular es instar al gobierno de españa a que en virtud del artículo once del tratado

se activen todas las gestiones diplomáticas necesarias para conseguir ese indulto para paco larrañaga por qué el indulto

una resolución en el año dos mil seis del comité de derechos humanos de naciones unidas donde se declaró injusto el juicio y

y se había vulnerado el artículo catorce del pacto internacional de derechos humanos hay pruebas importantes que no pudieron ser utilizadas o que fueron desestimadas por el tribunal filipino en aquel procedimiento judicial que tuvo lugar y

hubiera sido declarado inocente como parece casi imposible conseguir la celebración de un nuevo juicio lo que se solicita es dado que esa gracia corresponde al gobierno de filipinas y existe un tratado bilateral

active realmente todos sus mecanismos diplomáticos toda su iniciativa política para tratar de impulsar el conseguir

de los años que lleva en euskadi en la cárcel de martutene cumpliendo su condena ha conseguido

pero en fin considera este grupo

porque es una persona que creo que merece ser declarado indultado por aquellos hechos que fueron injustamente juzgados

y a su consideración esta proposición no de ley para impulsar las gestiones diplomáticas encaminadas a la consecución del indulto de paco larrañaga nada más y muchas gracias

gracias señora presidenta muy buenas tardes tal y como se ha dicho no es la primera vez que este parlamento se posiciona en relación con la situación

larrañaga ya en dos mil cinco el grupo popular el grupo parlamentario popular presentó una proposición no de ley en la que instábamos

de españa solicitara el indulto una

a una declaración institucional aprobada por todos los grupos del parlamento

del gobierno de españa y de las instituciones era la de evitar

y lograr su liberación la única que en ese momento tenía la posibilidad de actuar era la presidenta de la república el gobierno español siempre contrario a dicha pena solicitó que fuese conmutada por la cadena perpetua

la presidenta en el año dos mil seis el señor larrañaga posteriormente fue trasladado a españa al amparo del tratado sobre el traslado de personas condenadas firmado entre filipinas y españa dado que

la audiencia nacional decidió convertirla en una pena de cuarenta años de reclusión el señor larrañaga solicitó en junio de dos mil diez el indulto de las

únicas competentes como ya se ha dicho para concederlo de acuerdo con el artículo once del tratado al que nos referimos en la enmienda de totalidad que hemos presentado dicho artículo once establece que solo el estado de condena podrá conceder el indulto

y sus leyes sin embargo el estado de cumplimiento podrá solicitar del estado

mediante petición fundada bien esta es la gestión que realizó el gobierno anterior el gobierno del señor

mediante una carta esa carta continua vigente tal y como explicó poco el ministro de exteriores a una pregunta

en el senado y por tanto la postura de este gobierno sigue siendo la misma es decir la de solicitar

ese indulto y por tanto son las gestiones

a cabo por el gobierno de mariano rajoy

estas gestiones en estas gestiones se está contando

de cuál es la situación y la enmienda que el partido popular planteaba

de esta proposición no de ley es que se consiga el indulto del señor larrañaga no tenía sentido y era

el que este parlamento entrara en si

el señor larrañaga pues es inocente o no ese procedimiento tuvo todas las garantías o no porque entonces quizás estamos poniendo más bien palos en las ruedas para conseguir lo que estoy segura que queremos en este día de hoy con esta iniciativa que es lograr el indulto por tanto la enmienda del partido popular

y centrarnos en lo que les decía es decir solicitar que

continúe con las gestiones y se logre finalmente ese beneficio para el señor

termino señorías dando las gracias a la proponente de la iniciativa porque ha sido fácil llegar a este acuerdo y sobre todo lo que hoy

unanimidad y ese acuerdo entre todos solicitando algo que yo creo que todos estamos buscando y que espero que el gobierno de españa consiga

únicamente para decir que efectivamente votaremos a favor de la transaccional que ha sido acordada agradecer a la señora mendia que haya traído este asunto a la cámara y

transaccional sirva para lograr cuanto antes el indulto del señor

asuntoan pero yo he encontrado también del mismo consejo del consejo de derechos humanos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

sobre la dispersión que se aplica a algunos presos que no exactamente a paco larrañaga por parte del estado español un hecho que en sí constituye un riesgo y una carga económica para los familiares que los visitan

en que los acusados que se encuentran en prisión provisional están internados a gran distancia de sus abogados el relator especial opina que la política penitenciaria española sobre los sospechosos y condenados por delitos de terrorismo pueden dar lugar a situaciones incompartibles con los objetivos de rehabilitación y reinserción social

de acuerdo con el párrafo tres del artículo diez del pacto cuando hablan del pacto hablan del pacto internacional de derechos civiles y políticos ratificado por españa en el año mil novecientos sesenta y seis y sigue ese mismo informe

de la prisión provisional y dice sobre la prisión provisional el relator especial recuerda que en el párrafo tres del artículo nueve del pacto se establece que mantener en prisión provisional a las personas que se encuentren a la espera de juicio por acusaciones de carácter penal

de que los plazos de la prisión preventiva se limiten de manera compatible con el artículo nueve del pacto

como criterio para determinar la duración máxima de prisión provisional espainiak euskal preso politikoen kasuan sistematikoki

egindako beste txosten bat sobre la detención en régimen de incomunicación sigue diciendo el relator de derechos humanos de las naciones unidas

explicar y para entender nuestro voto positivo a la enmienda de transacción soy demócrata y vasco mi gestión respondió a esos dictados

una vida humana es el tesoro más grande del mundo salvé las que pude estas frases que yo evidentemente suscribiría aunque no son mías y firmaría al cien por ciento son frases que pronunció hace setenta y cinco años el entonces ministro de justicia

con los derechos humanos por lo que vamos a apoyar la demanda al gobierno español para que solicite el indulto de paco larrañaga al gobierno

las frases de irujo no son recientes él las comentó en el año mil novecientos treinta y ocho

y es que el nacionalismo vasco siempre ha tenido un comportamiento centenario de respeto a la libertad y a los derechos humanos no solamente en euskadi sino en cualquier lugar del mundo donde existiera un ser humano hace ocho años este parlamento aprobaba una declaración institucional en la que solicitaba el indulto de paco larrañaga

aquella declaración se realizaba tres días antes justo de la celebración del día internacional contra

pocos meses más tarde la presidenta filipina conmutó dicha pena de muerte por la de cadena perpetua

estuvo su efecto positivo aquel parlamento vasco del año dos mil cinco hizo cuatro peticiones en primer lugar manifestar su apoyo y solidaridad

plagado de irregularidades en segundo lugar manifestar su solidaridad y compasión por las víctimas de los delitos y sus familias y declararse en sintonía con los principios adoptados en la declaración universal de derechos humanos que la pena de muerte no debe ser utilizada por los poderes públicos

en tercer lugar solicitaba la presidenta de filipinas gloria macapagal arroyo en ejercicio de las facultades que le otorga la ley del perdón el indulto o en su caso la conmutación de la pena de muerte para paco larrañaga

solicitada que sería el traslado de dicha declaración a la presidenta de filipinas

confiemos en que ahora ocho años más tarde ocurra lo mismo con esta propuesta y paco larrañaga pueda dentro de pocos meses pasear libremente por las calles de euskadi y estar entre nosotros sin que lo impidan los barrotes de la cárcel de martutene respecto a la intervención de eh bildu yo creo que muchos estamos en grandísima parte

me gustaría que me aclarase el portavoz del partido nacionalista vasco en qué parte

está de acuerdo si en la parte en la que la justicia española vulnera derechos fundamentales

me preocupa bastante que un partido que tiene responsabilidades de gobierno en el país vasco y que tiene parte de la política penitenciaria entre su gestión plantee estas dudas

que podremos pensar que es mejorable podemos decir como decía churchill que la democracia es el menos malo de los sistemas pero creo que

que el tiro en la nuca de la que hemos estado padeciendo en este país durante muchos años

que le haya tocado a usted hacer este papelón porque yo desde luego no tengo ninguna duda sobre su trayectoria democrática y sobre su condena

pero me gustaría que este punto por ejemplo lo hubiera llevado otra persona en su grupo quizás con otra trayectoria histórica y otras mochilas a la espalda

y salirse de la cuestión porque aquí lo que nos ha traído hoy al pleno es la situación de paco larrañaga yo creo que todos los que hemos tenido ocasión de conocerle y los que no por la prensa

y con su situación penitenciaria y creemos que se merece si no

por lo menos un indulto que le pueda dotar de una nueva oportunidad en la vida

o no y la socialización y la inserción social de los presos vascos compete fundamentalmente
a esa doble condena que han venido padeciendo en las cárceles mendia zuk

por centrar el tema que nos ha traído hoy aquí que parece que concita el acuerdo de toda la cámara que es lograr

la conmutación de esa pena el que el señor paco larrañaga pueda estar

durante todos estos años es por defender las libertades y defender el derecho

de la pena de muerte cosa que hay algunos que no lo pueden decir tan claro

ha hecho una similitud entre el partido socialista y el partido popular aquí le dijo la sartén al cazo ustedes también cogen las cosas que les apetece pero por centrar el tema y porque creo señora presidenta que si hubiera cortado antes la intervención

sobre todo porque me parece que en esta cámara lo que tenemos que hacer es respetar

a lanzar su mensaje todos podríamos hacer lo mismo y entrar ahora en debates que no vienen a cuento no lo voy a hacer

sobre esta iniciativa y tendremos tiempo de debatir sobre otras cosas

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den ramírez jaunak dauka hitza señora mendia quería decir que me refería simplemente no a los derechos

con el caso de paco larrañaga y quería decirle que me refería en concreto a la primera parte del señor maeztu cuando ha hablado del alejamiento yo creo que en esta cámara casi todos estamos de acuerdo que el alejamiento de los presos ahora puede ser una conculcación de los derechos humanos me refería simplemente al alejamiento y

de otros derechos como pueden ser los políticos jurídicos o sociales eskerrik asko ramírez

buenas tardes gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios

existe un acuerdo mayoritario en relación con esta cuestión es una cuestión

el once de octubre de dos mil seis habló de este tema conoció esta cuestión y dijo

a que proceda a la puesta en marcha coordinación en su caso redacción de un estudio global sobre la realidad

progresivamente la dotación presupuestaria en un plan plurianual para las subvenciones a los centros de enseñanzas musicales a cuya financiación contribuyen las administraciones públicas locales para alcanzar en cinco años el treinta y tres por ciento

sigue siendo y también decía la iniciativa aquella que en cualquier caso dicho departamento adoptará las medidas precisas para aplicar parte del gasto aprobado en su presupuesto actual y que no se hubiesen ejecutado al final de ese ejercicio incrementar la partida para las escuelas de música bien todavía hay camino que recorrer

esos más de cinco años hoy hace falta darle un nuevo impulso a esta declaración

el contacto con la asociación de escuelas de música vasca

es de mencionar lógicamente el papel que desempeñan nuestras escuelas de música en la educación para todos integrando en sus planes pedagógicos oferta educativa para todas las edades y capacidades estilos musicales incluso deviniendo un foco de descubrimiento de conocimiento y de fusión de la historia y patrimonio musical de euskadi desde mil novecientos noventa y dos

de música ochenta y nueve centros en la comunidad autónoma vasca en la actualidad la enseñanza musical ha ido experimentando un gran auge plasmándose en el número de alumnos

en estos momentos ampliando la oferta de especialidades teniendo gran variedad de agrupaciones

con gran proyección en la cultura local y en la presencia

datos objetivos están ahí lógicamente

hay que compararlas también con europa al igual que ocurre en el resto de países de la unión europea desde hace mucho

protagonista decisivo en la educación musical de nuestro país también en el siglo veintiuno proporcionando modelos

que impulsen también dentro de esa educación en las artes el respeto social la apertura a la diversidad cultural eso es algo que tratan de favorecer también estas escuelas musicales es decir

el grupo proponente nosotros el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos hemos llegado a una enmienda de transacción que dice lo siguiente

y cultura del gobierno vasco a establecer un plan de acción a avanzar progresivamente en el marco de los recursos disponibles con el objetivo de alcanzar en un plazo a tiempo a determinar que también comparten algunas un poco generales pero las propias escuelas en ese ámbito de que

a determinar una financiación estable del treinta y tres por ciento para las escuelas de música y a colaborar con la asociación de escuelas de música del país vasco para la mejora

una consolidación del sector de la educación musical bueno efectivamente

es genérica hay un compromiso del gobierno vasco de actuar de colaborar con las escuelas musicales ellas han entendido esta cuestión como positiva y en ese sentido solicitamos el respaldo

es más una declaración no es un compromiso aunque dice que el gobierno se compromete a ello no sé donde está el compromiso del gobierno pero bueno

establecer un plazo de acción pero datarik en un plazo de tiempo a determinar lehen behintzat jarri zen

hain zuzen hemen esaten den plan de acción hori egiteko y avanzar progresivamente avanzar progresivamente desde un punto

del dos mil doce pero ni eso se ha recogido helburuarekin bat gatoz

sí muchas gracias señora presidenta efectivamente pues para agradecer a los grupos el apoyo a esta enmienda de transacción

no era quizá el objetivo final o que todos hubiesemos querido como elemento fundamental o final pero sí que es cierto que

nuestra labor la labor de los grupos parlamentarios estará controlar la acción del gobierno que sí que establece un camino de actuación en relación con la colaboración con la financiación de las escuelas de música

mediante esta declaración institucional el parlamento vasco reconoce

de los derechos de estas personas y de promover las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y oportunidades la equidad y la no discriminación social sanitaria educativa o laboral ante el hecho de que las personas que sufren enfermedades poco frecuentes

de la crisis económica que estamos padeciendo el parlamento vasco se compromete a seguir impulsando acciones para garantizar el cumplimiento del principio de equidad

afectadas por enfermedades poco frecuentes y sus familiares de tal forma que se cubran sus necesidades en igualdad con el resto de la ciudadanía